gracias señora presidenta señora

vemos que se trabaja que se ponen en marcha que se

y que hay en teoría un trabajo en relación con el desarrollo de esos programas de esos proyectos

decíamos que la comisión interinstitucional que participa en ese proceso de elaboración y consenso del documento estuvo formada por el gobierno vasco por las diputaciones forales de álava bizkaia y gipuzkoa por los tres ayuntamientos principales eudel

que las instituciones pactan esos veinte proyectos culturales y desde luego usted se acaba de referir a un proceso de entendimiento

porque gipuzkoa la diputación de gipuzkoa el ayuntamiento de san sebastián parece que no va o parece que se ha descolgado del trabajo interinstitucional

nos llama mucho la atención y le queremos preguntar

en esta comisión interinstitucional en estos grupos de trabajo porque

que aparte del sector privado a parte de los artistas o de los

políticas municipales culturales y algo pasa en gipuzkoa entonces es decir nos preocupa

esa preocupación qué pasa que hay problemas con el asunto de la capitalidad cultural y los tratan de trasladar a otros ámbitos culturales

culturales o hay vagancia cultural por parte de alguna institución es decir está claro que siendo un proyecto

nos preocupa algo está fallando efectivamente nosotros entendemos que hay que participar y sabemos que lo está haciendo decididamente la diputación foral de álava y el ayuntamiento de vitoria

tratando de trabajar en conjunto con el resto de instituciones y con el gobierno vasco y lo está haciendo constructivamente como usted lo sabe

fase de discusión pero también también pero qué pasa en gipuzkoa

digo por parte de las instituciones forales o municipales es decir ya vemos como el proyecto del capitalidad cultural dos mil dieciséis va renqueante esperemos que ahora tenga algún impulso

pero aquí no parece que se trabaja nos transmiten esa preocupación pero yo supongo que habrá alguna reflexión kultura auzolanean tiene

institucionales en todos sus niveles dinamizar las dinámicas intersectoriales y transversales que crean sinergia garantizar un tratamiento preferente al impulso de contenidos y servicios en euskera hacer

impulsar la incorporación la integración social la diversidad cultural ofertas de servicios culturales integrar al sector a la iniciativa privada

y se está trabajando por qué gipuzkoa y su capacidad cultural se descuelga de esta cuestión muchas gracias

realmente me sorprende señor barrio

y venimos aquí a criticar qué es lo que hacen las instituciones guipuzcoanas en relación a la cultura yo sé que no han participado en todas las reuniones pero

yo no creo que exista problema y en todo caso se lo debería preguntar a ellos mismos

no creo que sea porque se descuelguen en ningún momento han dicho que se descuelguen no lo han verbalizado ni lo han indicado ni porque la cultura en guipuzcoana se esté cayendo yo creo que eso es

de otro análisis totalmente distinto al que yo creo que nos traía hoy aquí es decir aquí hemos explicado cuál es el desarrollo del proyecto kultura

hemos dicho de todo el gran trabajo ingente que se está realizando en el que participan un montón de personas

de las distintas instituciones y como he dicho al principio se trata de un plan en el que acordemos cuáles son

las iniciativas en las que tenemos que colaborar donde podemos tener sinergias e impulsar proyectos y estamos trabajando en ello yo creo que la descripción que se ha dado de fechas recientes porque desde que se aprobó en el consejo vasco de la cultura el veinticinco de junio el programa kultura auzolanean desde luego el número de reuniones y de puesta en marcha de todos los proyectos yo creo que es de destacar y lo mismo que en estos días de año así mismo se van a celebrar todas las reuniones previstas

no lo sé porque como solamente me ha citado qué pasa con gipuzkoa pues ya no sé si seguir con kultura auzolanean o decirle pues bueno tendremos una reunión con los responsables culturales guipuzcoanos y luego ya le informaremos

como le iba diciendo considero fundamental hacer hincapié en la fuerza en el consenso

otorgando el plan kultura auzolanean intentaremos incorporar

y también hemos comentado igual nos tenemos que desplazar allí mismo hacer las reuniones puede ser una idea y hacer unas reuniones itinerantes también es otra propuesta muy interesante

un instrumento para acordar con los agentes públicos y privados la visión estratégica un plan que aborda la totalidad de veinte proyectos priorizando una visión realista actual y pragmática y con el objetivo de lograr

este mismo año respecto al resto de los proyectos que no he citado en la primera intervención se prevé poner en marcha los otros nueve proyectos y grupos de trabajo antes de finalizar este presente año

completar la red de lectura pública impulso del observatorio vasco de la cultura como referente de conocimiento comenzaremos también con la elaboración de un nuevo mapa subvencional en el ámbito del teatro la ley de patrimonio cultural el proyecto de creación de la oficina de música

del modelo de red sarea y la adecuación a la situación actual los nuevos modelos de negocio audiovisual y de cine en euskera trabajo en torno al sector de libro y la digitalización y así mismo se abordará el proyecto

en la comisión interinstitucional celebrado este mismo miércoles como usted ha citado hemos tenido la ocasión de presentar todos los pasos dados las reuniones celebradas

en todo caso el próximo diez de diciembre está prevista una nueva reunión de la comisión interinstitucional en la que se prevé una mayor avance en los proyectos y por tanto también una mayor concreción de resultados y logros obtenidos

así mismo se prevé la elaboración de un informe periódico que se ha publicado a través de la página web de kultura auzolanean

al estado del plan y de los proyectos actualizada en todo momento bukatzeko barrio jauna kultura auzolanean planaren oso balorazio positiboa egiten dugula esango dizut

sailburua bueno pues hablamos del guggenheim de bilbao y mucho me temo que

del guggenheim me va a decir usted que aun no se ha firmado totalmente el acuerdo no se ha rematado totalmente pero si yo le interpelo hoy consejera es porque

el grupo socialista está muy preocupado de verdad muy preocupado por

respecto a la marcha de la negociación tengo que empezar diciendo que el museo guggenheim bilbao es un éxito

proyecta la imagen de bilbao en el exterior atrae turismo especialmente extranjero la mayor parte de los visitantes son

y tiene un valor artístico indudable la última colección que hemos tenido ocasión de ver a partir de la última semana es francamente buena

que casa muy bien con el propio edificio en definitiva digo por zanjar este asunto el grupo socialista cree que es muy bueno que es necesario que el museo guggenheim de bilbao

su andadura dicho esto también creemos como creíamos hace un año como creíamos hace dos que hay factores que es necesario mejorar que hay cuestiones que es necesario introducir

en esta negociación y fundamentalmente están integrados

una mayor presencia vasca en el gobierno del museo en la capacidad de decisión

en la capacidad de decisión sobre las exposiciones que se hagan y otra también muy importante en relativa a que en esta negociación el punto de partida no puede ser igual que el de hace veinte veinticinco años

ahora ya la marca guggenheim aporta a bilbao probablemente menos de lo que aporta el guggenheim bilbao a la marca

la red de museos guggenheim durante los últimos veinte años no ha tenido un éxito como el de bilbao podemos hablar de guadalajara

podemos hablar de multitud de ejemplos que han sido proyectos nonatos

un éxito que algo tendrá que ver con la ciudad con el entorno socio económico y cultural con la pertenencia a la unión europea algo tendrá que ver

bilbao y su entorno y por eso digo que no podemos partir en una posición subalterna como ocurrió hace veinticinco años en esta negociación en aquel momento éramos de bilbao ya pero la cuenta fue muy alta y no solo en dinero que en punto de partida fue cien millónes de dólares no no

porque es que pagábamos la ronda nosotros las administraciones vascas solo se reservaron el derecho a pagar

a decidir es verdad que el cincuenta por ciento cada uno pero uno es el pagano y el otro es quien decide son cuestiones distintas ejemplos

el acuerdo firmado en el noventa y uno en el que se reserva la gestión el nombramiento de los cargos directivos la política de compras la política artística la fundación solomon de nueva york y las administraciones vascas incluso no solo para gestión

que no está nada mal a parte de todos los gastos iniciales por cierto

tenemos que pagar otra vez por la marca que no lo sé fueron veinte millónes

en su inicio nos preocupa de todas las formas y por eso estamos hoy aquí

hoy le interpelo consejera porque en sus declaraciones cuando han dicho que ya están avanzadas están comprometidas ya

ustedes resaltaron algunos aspectos del éxito económico y de mejoras en algunas compras

pero no dijeron nada absolutamente nada de una mejora en la capacidad de decisión de las instituciones vascas dentro

ni de una mayor por no decir ya alguna relación con el arte vasco el tejido cultural vasco la impronta vasca en el museo no dijeron nada y si eso estuviera previsto para rematar dentro de mes y medio

fundamental porque es lo mejor que podían vender porque el éxito está conseguido y más me ha preocupado porque antes de ayer he escuchado una conferencia al señor vidarte al director del museo decidido también por la fundación solomon de new york y que tiene

que sigue pareciendo insostenible en la red guggenheim y en el museo específico de bilbao y le oí decir en una conferencia que

todo desde una perspectiva internacional pero

en ningún momento nada respecto a la capacidad de decisión de las administraciones vascas que siguen pagando no dijo nada respecto al arte vasco a la necesidad de aumentar

en fin en el museo a que siquiera apareciera algo vasco en la parte exterior del guggenheim cuando los paseantes

que tampoco ahí está la presencia vasca ni en un detalle es que no hay es que no hay pues cuando usted no lo dice la diputada foral de cultura de bizkaia no lo dice y el director del guggenheim no lo dice es

es que no hay y espero que me equivoque espero que usted me pueda dar una información de verdad lo espero sinceramente

unidos que corrija estas dudas estos miedos

si no es así tendrá nuestro apoyo caluroso si no es lo que yo he dicho y por eso le pregunto concretamente

en la renegociación del acuerdo sobre el museo guggenheim bilbao está usted defendiendo las recomendaciones de la ponencia parlamentaria

fue un gran esfuerzo de este parlamento que representa a toda la ciudadanía vasca su informe fue votado por amplia mayoría se sustentó en la opinión de expertos cualificados

y la dirección museística vasca y la universidad vascas

que orienta lo que yo le he resumido en la exposición anterior la necesidad de avanzar en determinados aspectos y es fundamental porque es un mandato del parlamento porque hace un año aprobamos una proposición no de ley

reafirmaba esa necesidad que el gobierno vasco haya caminado o esté transitando por esos senderos marcados por la ponencia para el bien de la cultura vasca y de la capacidad de decisión que también es económica no solo en decisión de las administraciones vascas voy a recordarle para terminar

recogía el informe hablaba en su primera recomendación de una renegociación del acuerdo de servicios de desarrollo y programación

y de forma que permitiera esa renegociación un contrato más equilibrado en la toma de decisiones y no en régimen de franquicia entre la administración vasca y la fundación solomon entendido por administración vasca gobierno vasco y diputación foral

pretendía establecer que se estableciera una colaboración paritaria y estratégica entre el museo guggenheim de bilbao y la fundación

que la fundación se comprometa a cumplir con la disposición acordada de dotar al guggenheim bilbao de una colección de arte vasco y español contemporánea adquirida con fondos

debe evitarse la desunión y la disparidad de criterios entre las instituciones vascas

debilitaban la posición negociadora por ello resultaba necesario solucionar previamente las discrepancias internas para unificar criterios

para alcanzar una posición común y una única voz que nos permita defender del mejor modo nuestros intereses y estos son los intereses de euskadi

en octubre de dos mil trece para poner de manifiesto una posición conjunta y una unidad de criterio

una posición que nos permita obtener las mejores condiciones para la renovación del acuerdo por tanto hemos trabajado conjuntamente hasta ahora y lo seguiremos haciendo también en adelante

los principios fundamentales que deben regir el acuerdo y en segundo lugar la realidad del museo guggenheim bilbao tras una fructífera trayectoria de veinte años resulta evidente

partimos de una realidad completamente diferente a la que teníamos en mil novecientos noventa y cuatro tres años antes de su inauguración

hacen que nuestra posición sea considerablemente más favorable que la inicial usted ha criticado en numerosas ocasiones el carácter de franquicia del museo guggenheim bilbao pero lo cierto es que el actual acuerdo de gestión responde a una postura sensata y prudente por parte de las administraciones vascas y por parte de la fundación

debido a la inexperiencia en este ámbito en aquella época no es justo criticar el modelo implantado de gestión compartida ya que ambas instituciones han sabido favorecerse de dicha relación

han ido modificándose en la práctica de modo que en la actualidad son muchos los aspectos que se gestionan directamente desde bilbao de hecho

llevados a cabo de manera autónoma o en colaboración con otras instituciones museísticas internacionales de reconocido prestigio como el moma el metropolitan

en consecuencia esa mayor autonomía práctica del museo guggenheim de bilbao basada en la experiencia adquirida y la capacidad de gestión demostrada tendrá su reflejo en la renovación del acuerdo

sino también el resto de las recomendaciones recogidas en el dictamen aprobado por el parlamento vasco en la pasada legislatura si bien algunos de los aspectos vienen siendo

en este sentido y al hilo de lo comentado con respecto a la realidad actual del museo guggenheim bilbao la renegociación se plantea desde una perspectiva de cooperación y colaboración donde ambas instituciones suman un conjunto diverso y plural formando un modelo más enriquecedor y competitivo en el difícil mundo globalizado actual

debemos entender este modelo como algo positivo de lo que nos podemos beneficiar

mantenga su propia identidad y su capacidad de interlocución propia estableciendo alianzas con otras instituciones

ello demuestra el grado de madurez institucional alcanzado por el museo de bilbao que en tan solo diecisiete años de trayectoria

con las grandes instituciones museísticas de mayor prestigio internacional en cuanto a la colección propia a lo largo de estos años el museo guggenheim ha logrado reunir un extraordinario conjunto de ciento veintiocho piezas y setenta y tres artistas

que cuenta con identidad propia y puede considerarse autónoma y significativa además se ha hecho especial énfasis en reflejar la presencia del arte vasco contemporáneo

y si le voy a reclamar una explicación porque me lo temía y ya siento que la premonición

ha hablado de cuestiones generales pero no ha concretado una sola cuestión respecto a los compromisos de la ponencia para decir en qué sentido

la capacidad de decisión porque ha hablado de coordinación en un mundo globalizado bueno esas cosas que se dicen antes decía aquello del marco incomparable cuando el alcalde hablaba ahora se habla de un mundo globalizado que no es decir

va a introducir usted en la negociación para que la capacidad de decisión de las instituciones vascas tenga alguna presencia porque ahora mismo habrá mucha coordinación mucha cooperación pero mientras no se modifique eso la capacidad de decisión es

y el señor anderson no es una hermanita de la caridad es un señor que conoce muy bien el mercado de la vertiente internacional sabe cómo se gobierna todo eso

no va a vender barata la piel del lobo es decir no encuentro ningún elemento de optimismo en lo que me ha dicho veremos

tenemos que seguir exigiéndole y ya anuncio entonces que seguiremos que introduzca una perspectiva no de sumisión sino de exigencia siempre

y no solo una frase retórica como usted ha utilizado

de fuerza porque aportamos tanto o más a la red guggenheim como la red aporta a la marca guggenheim

sino para la red guggenheim ha hablado usted

después de decir que estamos en mejor posición de que se ha criticado de que he criticado en varias ocasiones que es una franquicia de new york claro puede resultar ofensivo para alguien que tenga sensibilidad me estoy refiriendo a las administraciones no a las personas y que las administraciones vascas sean

una sucursal en su capacidad de decisión

es verdad pero es que no lo digo yo lo dice la ponencia en su dictamen aprobado

en este parlamento y fundamentada en hechos ciertos como son que nosotros pagamos y ellos deciden se resume muy fácilmente nosotros pagamos y ellos deciden por un enumerar en qué cosas porque conocemos todos y se va el tiempo por eso es una franquicia

sobre el relato artístico del museo sobre la colección porque la parte vasca no está presente

en la capacidad de decisión y porque quién podía defender nuestros intereses tiene dos sombreros uno el del guggenheim como director y otro

como responsable también de la red guggenheim hay

eso es así eso se va a arreglar desde ya que hace años que venimos diciendo que es un problema mire en el acuerdo que ahora nosotros queremos que debe ser renegociado hay como ustedes saben muchísimos artículos pero hay solo un apartado que voy a destacar que dice

una colección de arte contemporáneo vasco y español seleccionada por la fundación solomon con

para sus adquisiciones con destino específico para el museo adquirida con fondos proporcionados por la fundación solomon guggenheim y prestada por la fundación al museo es decir ya no puede haber

de arte vasco y español dónde está veinte años después

en presencia suficiente no en número de obras sino en términos relativos respecto al coste de las obras que

dónde está esa impronta vasca en el museo guggenheim qué está usted defendiendo en esta negociación en ese

de primer orden de la red guggenheim un análisis detallado del acuerdo de gestión y de la evolución practica de las relaciones existente demuestra que no existe

sino que al contrario configura una estructura equilibrada en la que ambas partes colaboran obteniendo múltiples ventajas y beneficios y garantizando en todo momento la autonomía de bilbao a través de una fundación que asume la gestión y dirección del museo

y de sus órganos de gestión sabe que es incierto que bilbao carezca de autonomía o que este supeditada a nueva york en las decisiones claves de su funcionamiento como su colección o sus exposiciones el hecho de que en bilbao algunas decisiones no se tomen de manera aislada sino conjuntamente con la fundación guggenheim se ha confundido con la existencia de una relación de dependencia

tanto las aportaciones como los intereses comunes hacen que busquemos y se establezca y se mantenga una relación de cooperación entre ambas instituciones desde sus propias identidades

que supone un modelo más enriquecedor y competitivo con respeto a la necesidad de una mayor presencia del arte vasco y español

la colección propia del museo guggenheim bilbao es el especial énfasis en el arte vasco y español en esta categoría la colección propia de bilbao cuenta con significativos ejemplos de obras de artistas vascos y españoles

y proyección internacional del total de ciento veintiocho obras que componen la colección propia del museo treinta y siete han sido realizadas por artistas vascos en esta selección quedan bien representadas tres generaciones de autores vascos

oteiza y chillida pasando por una generación intermedia a la que pertenecen nombres como cristina iglesias txomin badiola

hasta los creadores jóvenes establecidos como javier pérez sergio pego

la mayor parte de las obras de arte vasco y español han sido compradas por la sociedad museo guggenheim de bilbao e incorporadas a la colección de bilbao por resultar de mayor interés para las instituciones vascas

respuesta a su compromiso de adquirir obras de artistas locales y desde el año mil novecientos noventa y dos ha incorporado en su colección veinticinco obras de arte de esta categoría además en estos diecisiete años ha organizado diecinueve muestras sobre la obra de artistas vascos nueve dedicadas a ellos en exclusiva

creo que hay una parte que se está llevando

de todas formas partiendo del consenso y en relación a una renovación continuista

los principios básicos que conforman el marco y que son los que se han puesto de acuerdo

son los siguientes prorrogar el acuerdo de gestión por un plazo de veinte años actualizando los contenidos del mismo con el fin de reflejar las condiciones operativas actuales

de la fundación ello permitirá otorgar una mayor autonomía de gestión y una mayor capacidad de actuación y decisión a las administraciones vascas

lo que permitirá al museo guggenheim bilbao definir como un nodo de primer orden en la red guggenheim

durante seis meses cada dos años y ello se hará sin cargo por gastos de desarrollo organización de dicha exposición de este modo se solventa la problemática suscitada entorno a las casas rotación de las colecciones que componen los fondos de la fundación proporcionar la colaboración del senior staff de la fundación solomon guggenheim para coordinar la gestión operativa del museo guggenheim bilbao incluir el museo guggenheim bilbao en la póliza global de seguro de las obras de arte de la fundación

quiero resaltar este punto desde la perspectiva de la internacionalización del arte vasco

con la creación y la investigación vasca y la difusión internacional y por último garantizar el nivel adecuado de aportaciones financieras de las administraciones vascas a la programación artística del museo guggenheim bilbao y a sus adquisiciones de obras de arte

señoras y señores parlamentarios señoras y señores consejeros

volvemos a hablar de la colonia nuestra señora de begoña de

constituye un conjunto formado por edificios con los jardines ciertamente singular por ser un ejemplo único en combinar a través de diseño la funcionalidad que su uso

asimismo a la vista de su interés histórico y social que no somos nosotros los que lo hemos reconocido sino expertos y especialistas

arquitectura neovasca que constituye ese complejo de urdaibai nos parece oportuna su protección legal nos parece oportuna a nosotros

al parlamento vasco en su sesión de la comisión de cultura de euskera y juventud y deporte

aprobó la proposición no de ley siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que disponga la apertura de expediente para la inscripción como viene inventariado en el inventario general del patrimonio cultural vasco con la categoría legal de espacio cultural del conjunto formado por los edificios y los jardines de la colonia nuestra señora de begoña de sukarrieta asimismo insta al gobierno vasco a que proceda a la incoación del expediente de declaración como

llamados edificio principal casa del guarda casa del director

mandato parlamentario es una declaración parlamentaria y sí que nos interesa saber la gestión la apertura de la gestión o los expedientes

una serie de vicisitudes judiciales frustraron la circunstancia nosotros tuvimos también la oportunidad de oír la comparecencia de la asociación abiña de sukarrieta y

que proteger bueno pues queremos saber qué ha hecho el gobierno vasco en relación con este

ondarearen legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen kultur espaziotzat jotzeko en consecuencia y por las tres razones mencionadas

una prioridad actual en el ámbito del patrimonio cultural la defensa protección

pero como comprenderá no podemos proteger todos y cada uno de los bienes que consideramos de interés cultural

es nuestro deber realizar un ejercicio sereno y responsable de priorización

los edificios y el espacio de las colonias conservados sí

en función del uso garantizan pero protegido entonces no conservado sí es importante pero protegido no y por eso le decía yo lo que la reflexión que hicieron quienes comparecieron aquí los arquitectos y gente de la cultura de la zona

lo que es único lo tenemos que proteger también decía que su arquitectura tiene alma vasca

esa referencia del estilo neovasco arquitectura serena

importantes y hay que buscar la protección desde luego cultural

con estos edificios y con estas realidades veremos la nueva ley y nosotros entonces trabajaremos porque este tipo de cuestiones este tipo de edificios

y desde luego podrá ser un buen marco de debate de esta cuestión y ahora entroncando entonces este debate la protección de las colonias de sukarrieta con el punto anterior y el punto siguiente

en las conversaciones de las renovaciones del acuerdo con la fundación salomon guggenheim para la posible extensión de la realidad del museo de bilbao

sukarrieta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio aunque quisiera usted vincular nuestra postura con la renovación del acuerdo con la fundación solomon guggenheim que a continuación trataremos o con la posible ampliación del guggenheim en el entorno de urdaibai debo aclarar que nada tiene que ver

no hay encaje legal posible para la protección de las colonias de sukarrieta

ez dituzte baldintza horiek betetzen además hay que añadir que no podemos considerarlo

en todo caso tal y como he mencionado en mi primera intervención nos encontramos en la actualidad en proceso de elaboración de una ley de promoción cultural

prevemos remitir a consejo de gobierno para su aprobación en el primer semestre de dos mil quince

dicha ley es precisamente ampliar las categorías de los bienes culturales objeto de protección conservación y difusión reforzando de manera especial la protección de nuestro patrimonio inmaterial podría ser efectivamente que la protección de las colonias sukarrieta encontrara mayor amparo en la nueva ley si bien aún es pronto

para finalizar quisiera subrayar que es intención de este gobierno establecer a través de la nueva ley los órganos de gestión y participación en relación con el patrimonio cultural eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta no quiero ser repetitivo con la

que ha presentado antes el señor reyes en la interpelación y me da la sensación además de que seguiremos hablando de este tema por el carácter de la iniciativa una interpelación suele tener una consecuencia

seguramente hablaremos pero sí que me gustaría no siendo repetitivo y además alabando que usted ha conectado desde el principio con el trabajo que realizó esa ponencia

el honor de participar de una manera muy constructiva pues

se ha llegado a lo que se ha llegado a este momento a este momento

con la fundación guggenheim y eso de alguna manera lo ha tratado de responder

sensación suya la consideración suya como miembro de las negociaciones y como persona fundamental en todo esto en relación con que si vamos a cambiar

ahora somos de tú a usted en relación con las relaciones instituciones vascas fundación

de tú a tú a ver si nos vamos a imponer de una manera mejor o más práctica y más

en esta institución tan importante para todos que es el museo guggenheim bilbao en relación con nuestro planteamiento y nuestra relación

y son para veinte años donde hemos aprendido muchas cosas señora consejera hemos visto

hemos aportado mucho y nosotros ahora yo creo que pedimos que se hace esa reflexión en relación con la trayectoria exitosa del museo usted nos diga que ahora vamos a ser de tú a tú

en primer lugar la unión de las administraciones vascas desde el inicio del proceso de negociación hasta el final del mismo y por supuesto también en adelante

y en esa unión es una postura única y es de colaboración

en segundo lugar y dado el gran éxito alcanzado por el museo guggenheim bilbao tomamos como base el criterio de continuidad y mejora

en sus diecisiete años de trayectoria el museo guggenheim bilbao ha cumplido satisfactoriamente los fines para los que fue concebido y ello ha sido posible en gran medida gracias

a medida que se ha ido ganando experiencia capacidad de gestión e interlocución internacional en cuarto lugar una mayor implicación de cara a la expansión y difusión del arte vasco de la mano de la fundación guggenheim eta horrez gain oso

eta no se trata de sensaciones señor barrio sino de acuerdos

gracias señora presidenta no cabe duda de que la sensaciones son importantes también porque estamos en un momento de construir los acuerdos por eso lo definitivo por eso le digo que la experiencia nos dice que

distinta se tiene que equilibrar en relación con lo que hemos visto que ha sido ha formado parte de la primera andadura de lo normal seguramente pero en ese sentido espero que ustedes hagan un acuerdo que sea equilibrado y desde luego donde mande más la parte vasca en relación con algunas cuestiones porque es que

mire ahora estamos en proceso de negociación de presupuestos para

no lo sé muy bien pero supongo que lo mismo eso van a ser en veinte años

por dos ciento cincuenta y dos millónes de euros ciento cincuenta y dos millónes de euros más o menos y algo más habrá

este año veinte años y veinte años también la diputación eso es un dinero para que nuestro peso y eso hay que tenerlo previsto ahora para que nuestro peso sea de tu a tu nuestro

factor de influencia relevante y decidido

la previsión de veinte años eso es mucho dinero

y queremos que haga usted y ustedes las cosas bien confiamos en ello eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

no tengo aquí los presupuestos del guggenheim del dinero que está usted hablando no es un dinero que se le da a la fundación y se acabó a modo de pago ni muchísimo menos el museo tiene que funcionar son los gastos de funcionamiento del propio museo por lo tanto estamos hablando de que no le estamos haciendo un pago a la fundación de ciento cincuenta y no sé cuantos millónes que ha hecho usted el cálculo en veinte años

y el funcionamiento del museo de la forma que está funcionando actualmente

internacional es un dinero necesario y hacemos realmente una apuesta porque eso es lo que revierte por lo tanto yo creo

estamos negociando hemos establecido unos principios sobre los que

esperemos alcanzar un acuerdo también en ese documento final y entonces

señora uriarte el pasado mes de septiembre finalizó el plazo de inscripción de la convocatoria de los centros públicos de educación primaria

para el desarrollo de proyectos básicamente trilingües plurilingües qué valoración hace usted su departamento

que usted también conoce en la medida en que se trata de un proceso de experimentación singular de repercusión social y de gran relevancia cuyos resultados nos han permitido avanzar en la convocatoria que hoy nos ocupa hoy sabemos que hay una correlación muy fuerte entre el número de horas de impartición de currículum en inglés y el progreso en nivel de idiomas sin perjudicar ningún otro avance por ello este gobierno continúa su apuesta

yo me alegro señora uriarte de que usted ponga en valor el met pero

porque me temo que dada la irrelevancia con la que ha pasado su convocatoria la inoportunidad en el tiempo de la misma su ambigüedad en el planteamiento del proyecto no tenga usted ni siquiera la necesidad de baremar muy poquitos centros han respondido esa convocatoria señora y la razón es muy sencilla

usted ha pasado una convocatoria a los centros justamente en su tiempo de verano una convocatoria del veintisiete de junio que ha concluido ahora en septiembre cuando usted ha pasado todo el curso doce barra trece

que ha supuesto cero para lo que ha sido la expansión del trilingüismo

justamente la saca usted en verano de manera muy inoportuna los centros se organizan y organizan precisamente sus horarios

en verano y cuando hay implicación curricular antes de marcharse para verano por tanto que llegue una convocatoria en ese tiempo que también afecta a créditos horarios de seis horas cuando usted los pide para marzo los proyectos nuevos significa

para el trilingüismo trece barra catorce sin nada para el trilingüismo

no obstante con los resultados que usted misma aquí ha mencionado

experimental del trilingüismo que lejos de perjudicar ningún otro contenido cuando el inglés es utilizado curricularmente incluso favorece el avance del euskera por ser otra lengua y esto está así comprometido en la evaluación científica pero es que usted además ha hecho que la convocatoria

su proyecto que ha salido desnortada no se sabía si era para la formación si era para la generalización progresiva del trilingüismo si los centros que precisamente atienden población social desfavorecida tenían algún tipo de incentivo para acudir a ella es decir

iban a contar ni si entraban con alguna línea o entraban con dos y nosotros sabemos que ustedes han llamado incluso a los del met que no pensaban

para afirmarles que entraran a la convocatoria porque si no retiraban recursos

que si usted cree en todo lo bueno que es el avance

usted lo que tiene que hacer es retirar la rueda de molino que ha puesto a todo lo que es la fase de modernización del sistema educativo y avanzar con mucha más convicción

con este proyecto que es importante no solo para nuestras escuelas sino para nuestro futuro en nuestro país

que lo haga que defina perfectamente el proyecto de generalización de extensión del trilingüismo y que no tenga ningún miedo

lo va a favorecer y usted lo sabe porque todos los resultados científicos así lo definen

parte de sus afirmaciones con respecto a la convocatoria de los centros públicos en primer lugar se convocó a todas las direcciones de los centros en un acto que tuvo lugar el cinco de junio al fin de informar de primera mano y con antelación suficiente la relación de la convocatoria

posteriormente se publicó en la página web en la resolución del veintisiete de junio y el plazo de finalización de las solicitudes en el caso de los centros públicos terminó el veintiséis de septiembre

los concertados ha terminado un poco más tarde digo que es un éxito sí porque es un éxito hay ochenta y dos solicitudes presentadas en la convocatoria de centros públicos nuevas diecisiete treinta y cuatro participaron también en el met y otras quince corresponden a proyectos plurilingües existentes con anterioridad

y además si hacemos la distribución como usted lo pedía en la argumentación decía

tengo que empezar afirmando y seguro que no le voy a sorprender de forma categórica que las personas de tolosaldea al igual que el resto de las personas de euskadi tienen garantizada

financiada y controlada de manera pública y a través de una estructura sanitaria en su propia comarca eusko jaurlaritzak pertsona guztiei inolako

al igual que en otras muchas hay servicios públicos provistos a través de empresas privadas muchos contratados desde sus ayuntamientos pero en lo referente a la atención sanitaria que reciben las personas

que en el resto de euskadi gestionar y prestar servicios sanitarios a las personas desde el sistema sanitario es responsabilidad del gobierno y no le quepa ninguna duda de que la vamos a seguir ejerciendo

y responsable y en este caso concreto para cumplir ese fin a día de hoy la mejor manera es a través de un centro sanitario concertado este gobierno y su departamento de salud están abiertos a hablar con los alcaldes de cualquier pueblo

porque entendemos que son los representantes más directos de las personas y porque respetamos sus funciones de hecho como seguro que usted sabe

y también con representantes de la diputación foral incluido su diputado no una ni dos veces ahora bien esto

que vayamos a constituir mesas de trabajo para cuestiones que consideramos que están bien resueltas con el mismo nivel de garantía que en el resto de las comarcas de euskadi

ubera andrea como usted bien ha reconocido el problema no está en hacer reuniones nosotros nos hemos reunido en multitud de veces el problema está en que nosotros no estamos

en una comarca a escasa distancia

un centro en este momento público como usted sabe el catorce de mayo el director de aseguramiento y contratación del departamento de salud el señor iñaki berraondo

presentó la cartera de servicios la evaluación de la calidad de su servicio

y también presentó una comparativa con los resultados con otras organizaciones de servicio equivalentes el informe revelaba con datos que los cambios efectuados

como de profundización de la atención integrada han supuesto mejoras

le sugiero que repase la comparecencia nosotros no pensamos dejar nuestra responsabilidad como departamento de salud en manos de otros y si alguien necesita una reunión que nos la pida ahora si el resultado de la reunión es que les demos la razón esto ya

la publificación de todos los recursos que integran nuestro sistema sanitario

solo obedece a un interés político no acorde con la mejora del servicio que prestamos a los ciudadanos uste dugu asunción klinikako hogeita hamabost

debido a la grave preocupante situación por la que está atravesando el aeropuerto hondarribia le queremos preguntar cuáles son las gestiones que usted está realizando desde el gobierno vasco

egun on berriro ere hay dos cuestiones claves

con el aeropuerto de hondarribia y son la declaración de excepcionalidad y del punto fronterizo en esos dos puntos hemos venido trabajando en los diferentes ámbitos en los que tenemos puntos de encuentro puntos de discusión con el ministerio y con aena

manifestando la necesidad de esas cuestiones desde que iniciamos esta legislatura en diferentes

del viceconsejero de mí misma hacia la ministra o hacia el secretario del estado hemos manifestando todas esas cuestiones y planteando

de manera inmediata además de eso también con relación a la

puesto que en ella están representadas las instituciones competentes del territorio como usted bien sabe desde el gobierno vasco diputación ayuntamientos

hondarribia también la cámara de comercio desde el dos mil trece ortxibia ha recuperado sus tareas de promoción del aeropuerto y en cuanto al comité de coordinación

trasladamos también públicamente que lo entendíamos como un primer paso para dar cabida a la participación de las instituciones para ir y se debe avanzar en un sistema descentralizado

en la reunión de constitución de este comité que fue el diecinueve de

pedimos expresamente la necesidad de completar el proceso de declaración de excepcionalidad así como avanzar también en los trámites que permitiesen acoger

y estas son las acciones que vamos realizando para intentar que los competentes permitan que funcionen correctamente eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora consejera los guipuzcoanos necesitamos tener un aeropuerto que sirva para los intereses estratégicos y la proyección internacional

sobre todo cuando en el dos mil dieciséis vamos a tener una capitalidad cultural de donosti san sebastián que va a hacer que muchos ciudadanos de europa vengan a visitarnos y sobre todo cuando el tren de alta velocidad está teniendo los retrasos que está teniendo en principio llegaba en el dos mil dieciséis

yo qué sé a lo mejor me voy de este parlamento defendiendo el tren de alta velocidad y todavía no llega los

de españa y de europa y a través de infraestructuras que se han competentes eficientes punteras como los socialistas reclamamos que creo que tiene que ser el aeropuerto de hondarribia y si usted

nos va a tener de la mano como usted ha dicho nosotros hemos presentado en esta cámara y en el congreso iniciativas

y para la declaración de la excepcionalidad cosa que todavía no está resuelta y no sabemos qué es lo que está pensando aena en ello

operativo sin necesidad de aumentar la pista pero lamentablemente señora consejera hay cifras que

en agosto el aeropuerto de hondarribia descendió un quince por ciento el número de sus pasajeros

sino cinco meses consecutivos tenemos de descensos y eso choca además con que este verano

gipuzkoa y donosti san sebastián ha tenido récord de visitantes por lo tanto qué deducimos de esto

no han venido a través del aeropuerto de hondarribia la conclusión es que no está cumpliendo la demanda de movilidad el aeropuerto de fuenterrabía que hay que darle una solución usted anunció señora consejera y esto sí que es de su competencia aunque no tenga la transferencia

con el resto de españa y con el resto de europa y no sabemos nada al respecto se ha quedado en un anuncio queremos saber señora consejera díganos

qué gestiones ha realizado qué nuevas rutas se van a implantar

vamos a unir san sebastián fuenterrabía con londres algo que se reclama desde hace mucho tiempo

de esos resultados o compromisos que haya podido usted llegar con algún tipo de compañía aérea

pero me ha nombrado las instituciones que lo componen no me ha dicho que actuaciones están llevando acabo dentro de esa sociedad por lo tanto señora consejera no sabemos

el aeropuerto de hondarribia agoniza se lo dije en una comisión usted preside el departamento más inversor de este gobierno y el que más puede transformar a euskadi pero lamentablemente como siga así señora consejera usted va a pasar a la historia de este gobierno por las paralizaciones del puerto de pasaia

y porque deja morir el aeropuerto de hondarribia qué casualidad todas son infraestructuras guipuzcoanas habría que mirarlo por eso señora consejera

que quedan dos años por delante y que usted trabaje para sacar adelante estas infraestructuras muy necesarias para gipuzkoa muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna oregi andrea zurea da hitza

jauna estamos trabajando en todas esas cuestiones que le he indicado a través de las sociedades y los comités y las reuniones en las que estamos presentes ortzibia comité de coordinación aeroportuaria relaciones bilaterales con el ministerio de fomento y con aena y etcétera

en unas mejores un poquito mejores condiciones operativas de cara a futuro en tanto que tenemos el tema del punto fronterizo sin embargo

para la supervivencia a medio y largo plazo y esperamos que tal y como se nos ha prometido en una carta esta declaración de excepcionalidad nos decía

que están trabajando en la preparación de toda la documentación para el proceso de certificación del aeropuerto el cual está previsto sea certificado en el mes diciembre del año dos mil catorce

los competentes en este aeropuerto cumplan con estas propuestas

y tenemos que ir paso a paso los dos puntos fundamentales eran el punto fronterizo la declaración de excepcionalidad se ha venido trabajando en esos aspectos y a la par en la promoción

por lo menos en las información en prensa poniendo

que en todo caso se trataba de circunstancia normales o habituales

la caliza es una roca sedimentaria compuesta de carbonato cálcico dura e impermeable pero soluble en agua

esta disolución es la que transforma la superficie estriándola en formaciones como lapiaz disolviéndola socavándola en cañones gargantas foces y cuando el agua se infiltra dolinas sumideros formando cavidades simas chimeneas cuevas los paisajes cársticos pueden quedar cubiertos por terrenos permeables o por otras formaciones

así mismo estas cavidades pueden quedar rellenadas posteriormente con otros materiales

con grandes diferencias mecánicas que se interceptan en los procesos de excavación de túneles no es

pero creo que es de todos conocido efectivamente cómo funcionan estos terrenos cársticos porque en nuestro territorio son muy habituales

realmente lo que quiero poner de manifiesto es que son altamente impredecibles eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea matute jauna zurea da hitza yo le agradezco la

uno tiene muy abandonados o muy olvidados sus conocimientos sobre esta materia

la educación secundaria y se lo agradezco pero me sorprende que nos hable de esto

sabido habitual no sé qué ha hecho gracia por ahí como algo sabido habitual

no se contemple a la hora de hacer los proyectos porque si es tan habitual y es tan fácil de reconocer y de saber cuál es la orografía del terreno en el que estamos y cuáles son

las cuestiones que puedan afectar por novedosas o no sobre ese mismo terreno no entiendo por qué se producen tantos sobrecostes no entiendo por qué esto que ha pasado lo del agujero de hernialde ha tenido

parece que el agujero económico del tav tenía que ser también agujero físico y parece que además se sabía que podía serlo tampoco nos parece que en todo caso y más allá del carácter imprevisto o no de actuar sobre un terreno tan complicado como parece que es el terreno de los macizos cársticos

no sean avisados durante dos semanas no nos parece qué hay de normalidad en eso porque si imprevisto es la aparición del socavón o del enorme agujero por lo menos previsible sería que se avisara a los municipios afectados

la reacción del gobierno ha sido que pasaran dos semanas para avisar de algo que ya estaban sufriendo desde hacía dos semanas lo encontramos demasiado razonable tampoco encontramos demasiado razonable o por lo menos dentro de un concepto de la habitualidad que no terminamos de entender muy bien el que en una rueda de prensa de los alcaldes de los ayuntamientos de la zona y de los representantes de la diputación foral de gipuzkoa que es la provincia en la que se ha

pues irrumpa y no se me ocurre otra palabra mejor porque en un todo terreno

no viene cogida por los pelos el viceconsejero a

y aprovechando ese momento yo creo que había tenido dos semanas para poder ponerse en contacto creo que había tenido dos semanas

y que no lo delegara por ejemplo en el jefe de obra de murias que era la empresa que lo estaba haciendo nada de eso se ha hecho con eso lo único que le queremos señalar y por eso tenía sentido la pregunta aunque fuera la última del orden del día y a alguna le pille ya muy cansada que

a los factores económicos a los factores de los sobre costes de las empresas amigas de los sobres que ejecutan la obra también ahora

la cuestión geológica apasionante por cierto ciencia es un problema típico de esta clase de formaciones y se aborda con garantías en los procesos de excavación de túneles a pesar de los reconocimientos del terreno y de las campañas geológicas que se realizan durante las diferentes fases de la construcción en estudios proyectos ejecución de obra la aparición de las cavidades es

siendo por tanto una circunstancia previsible de forma genérica en el momento de abordar la excavación y donde se aplican las soluciones técnicas al uso en la situación precisa durante la ejecución del túnel

se dio la circunstancia de una cavidad de gran verticalidad no detectable en primera instancia cubierta por otra formación geológica que colapsó en el momento de vaciar el material que rellenaba dicha sima en cualquier caso esta incidencia no ha supuesto un riesgo adicional a la ejecución del túnel que es estable en su conjunto

para la corrección de esta problemática restituyendo el terreno a su situación inicial

es una cuestión es un problema predecible en su conjunto por la zona en la que estamos pero impredecible en qué punto en qué momento o de qué manera se va a hacer eso sí

tenemos los medios técnicos para solucionarlo y para no tener problemas de seguridad en ese punto y ha estado garantizada todo el tiempo por otra parte y en cuanto a las relaciones con los

autorizó el corte durante mes y medio desde el seis de octubre hasta el veinte de noviembre y después lo que se pidió fue una ampliación de esa una ampliación

se han explicado las afecciones al municipio las actas previas los temas de depósitos de sobrantes

etcétera y en cuanto a irrupción o no el diputado general de gipuzkoa señor martín garitano me comunicó a mí personalmente el viernes que iba a ir a la obra y fuimos a